y espero no ser reiterativo ni redundante porque del fraude que pretendemos hablar en esta hora es de un fraude masivo de un fraude que el escudo a todo un sistema de explotación y hablamos del fraude en la contratación temporal en general en toda la contratación laboral se producen fraudes sean en contratos

a falsos autónomos me refiero también a contratos a tiempo parcial que esconden jornadas a tiempo completo pero nuestra iniciativa de hoy habla de los contratos temporales

nueve de cada diez contratos que se realizan en la actualidad son temporales el abuso de la contratación temporal es un hecho incontestable solo tiene que entrar en internet y buscar contratación laboral fraudulenta y verán

por otra parte el hecho de que la transacción que hemos alcanzado una serie de grupos en este asunto sin mayor esfuerzo denota que existe esa conciencia de que la contratación temporal esconde claramente situaciones fraudulentas aunque los datos que tengo no me concuerdan se habla de que en españa se meten a la semana más de diez millónes de horas ilegales de las cuales el cincuenta y cinco por ciento de ellas no

en euskadi que tiene una tasa de temporalidad inferior a la media española sin embargo estamos a la cola en la conversión de los contratos temporales en indefinidos por lo tanto

o de servicio determinado o de trabajos en prácticas para la formación de relevo de interinidad

otra forma de contratación fraudulenta afectan no solo a las empresas también a la administración pública y esto es importante que lo tengamos en cuenta

habla sobre todo de dotar de medios a la inspección de trabajo pero la inspección de trabajo debe de tener también en cuenta que en la administración pública se producen a veces estas situaciones con más frecuencia de la deseada mañana uno de mayo día del trabajador en el que

el derecho a trabajar en condiciones dignas y hoy en vísperas de esa fecha

que debiera de hacer ver a los ciudadanos que realmente las instituciones están entregadas y aplicadas a la tarea de efectivamente acabar con esta lacra del fraude

denota por otra parte que efectivamente hay esa conciencia como digo de que existe en buena medida

un fraude en la contratación damos por supuesto que en el parlamento se pueden tratar de todos los temas de todos los asuntos que los grupos quieran plantear y hoy a la mañana entre otros se debatía sobre los destinos de la patria en una discusión que parecía más de galgos y podencos mientras que los perros

y también del fraude en la contratación están ya mordiendo rabiosamente a nuestra sociedad y por eso traemos nosotros esta iniciativa para hablar de cosas concretas y de acción concreta señor lehendakari

en su momento los socialistas ya planteamos hace no mucho un par de meses

la convocatoria todavía no ha salido había también un compromiso del consejero de trabajo anterior en el cual se hablaba de incrementar incluso las plazas en la inspección eso todavía a día de hoy tampoco ha salido entendemos que es importante y la finalidad del acuerdo habla en esos términos de reforzar el cuerpo de inspectores de trabajo para que pongan remedio pongan fiscalización pongan ojos a todo este tipo de contratación

vemos que las gestiones que se han hecho hasta el momento pues no son visibles y entendemos que aunque el acuerdo habla de tres meses

lleve a cabo este tipo de acción política porque es que de lo contrario realmente

fracturada ya no entre los que tienen trabajo y los que no sino aquellos que incluso teniéndolo realmente no lo hacen en las condiciones mínimamente dignas y desde luego así como hoy los titulares de la prensa hablaban de que el despegue económico en este ejercicio parece que es importante tenemos que decir los socialistas

ni riqueza sobre condiciones de explotación porque no son meramente infracciones al orden social como se llama jurídicamente es que son verdaderamente delitos

en las que se maquillan este tipo de contratos por lo tanto entendemos que hay que ponerse manos a la obra

lamento que el señor maneiro de upyd no haya suscrito la transacción no por otra cosa más que porque realmente creemos que es un acuerdo fácil de adoptar y entendemos que habría dado

entiendo que en todo caso quizás en fin apelo al menos a su

en todo caso hoy en las instituciones mañana en la calle los socialistas vamos a reivindicar el derecho a los trabajadores a trabajar en condiciones dignas este es un tema que daría mucho de sí daría mucho de sí y se podría hablar de las mil maneras en las que

pero seguramente en la cabeza de todos nosotros cabe más de un ejemplo por lo tanto no me voy a extender en esa casuística pero eso es un hecho cierto que los grupos aquí presentes comparten

nos felicitamos por el acuerdo alcanzado y esperamos que el mismo se traduzca en una acción concreta del gobierno para poner fin y remedio a esta situación nada más y muchas gracias eskerrik asko

en nuestro caso desde que recibimos la iniciativa nos parecía de entrada que era más que razonable y la enmienda que presentamos únicamente era una cuestión de matiz porque al hablar en la propuesta de campaña parece que iba implícito

de algo limitado en el tiempo las medidas que había que tomar

el hacer una campaña nos parece bien creemos que hay que evitar a toda costa la precarización del empleo y desde luego con contrataciones temporales fraudulentas el empleo es precario

y que pudiera tener continuidad y los recursos y los medios que

establezcan para hacer frente a ese control

efectivamente finalmente no he firmado la transaccional mantengo

la enmienda de totalidad que es una enmienda que está muy bien está muy bien redactada plantea cosas interesantes y creo que es más completa que la transaccional que ustedes han firmado pero en todo caso no tengo fuerzas para defenderla a estas horas del pleno no tengo fuerzas para defenderla ni tengo fuerzas sobre todo para convencerles a ustedes sobre la bondad de mi enmienda y puesto que hay un acuerdo

amplio que ustedes han firmado se puede decir que también está bien votaré finalmente la transaccional y así doy más brillo al consenso y a la aprobación de esa iniciativa y de este modo también posponemos para una ocasión mejor el debate sobre lo que proponíamos en nuestra enmienda el contrato único indefinido

pero que necesitaría más fuerzas para defenderlo más calma más tiempo

en otro pleno pudiéramos debatir sobre la cuestión gracias eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkaria zulaika andrea zurea da hitza

lehendakari legebiltzarkideok arratsalde on nos traía esta iniciativa el señor itxaso preocupado por el reflejo de prácticas fraudulentas que en ocasiones se dan dentro de la contratación temporal

como pudimos escuchar ayer en la sesión de control al gobierno en el congreso de los diputados

y le cito apostar por la temporalidad y la precariedad es simplemente nefasto desde nuestro grupo parlamentario compartimos esta cita

como siempre se ha hecho desde el partido nacionalista vasco se lucha día a día contra la precariedad y la temporalidad

y por lo que se apuesta firmemente es por la estabilidad laboral

que son sin duda base de cohesión social y de progreso común supongo que usted señor itxaso es una suposición mía presenta esta iniciativa en esta cámara en línea con esa campaña que algunos de sus medios de referencia han denominado ofensiva del psoe en materia laboral

sobre la desigualdad en las condiciones de trabajo y continuará según se anuncia con iniciativas encadenadas del señor simancas de la señora gonzález veracruz

centra su proposición no de ley en la actividad de inspección de este gobierno en materia laboral en concreto en el ámbito de la contratación temporal fraudulenta

es conocedor de una muy importante materialización de la apuesta de este gobierno vasco por la estabilidad laboral y las condiciones del trabajo dignas como son las actuaciones que se realizan

usted señor itxaso es conocedor que las actuaciones de la inspección del trabajo

y con carácter prioritario en el ámbito de las contrataciones temporales en las últimas fechas hemos podido debatir en pleno como se comentaba anteriormente en relación a la inspección sin remontarme más ya el uno de diciembre pasado el consejero aburto nos hablaba de refuerzos específicos de la inspección basado en dos tipos de medidas por un lado medidas de refuerzo de la plantilla

sobre las medidas de refuerzo de la plantilla ya pudimos debatir ampliamente en el pleno

sin entrar en detalles sobre estas medidas creo que están perfectamente resumidas por el consejero toña en el reciente pleno de control del pasado viernes

monográfico de noviembre pasado esta interpelación se refería en concreto a tres de las cincuenta y cinco propuestas de resolución

la resolución número ocho hacía referencia a la inspección en su respuesta el consejero recordaba que la lucha contra la precariedad y la explotación laboral en todo ámbito en el que se produzca es objetivo prioritario de este gobierno para lograr ese objetivo se cuenta con la inspección de trabajo como herramienta fundamental que entre sus cometidos tiene la vigilancia y el control de las condiciones de trabajo

contra el empleo irregular y asegurar el empleo de calidad que señala la normativa señaló así mismo que se dispone de una plantilla de funcionarias y funcionarios

lo que condiciona las decisiones en esta materia no obstante al objeto de mejorar el trabajo de la inspección atendiendo a la demanda del parlamento se ha realizado un esfuerzo efectivo y se han incorporado tres inspectoras para reforzar las inspecciones territoriales así mismo

el resto de las vacantes además se ha iniciado un proyecto que supone el aumento de otras seis nuevas plazas de inspectores lo que va a permitir una mejor vertebración de la estructura en orden a desarrollar las funciones de control y la vigilancia de las relaciones laborales en cuanto a las medidas de refuerzo de la actividad de la inspección

de la cuestión que hoy tratamos he sabido porque así se ha informado en esta cámara

dentro de una formulación coherente de estrategia de fiscalización del cumplimiento de las normas laborales además se ha diseñado y actuado en campañas específicas

en la contratación temporal y de cumplimiento en materia salarial este plan de refuerzo este plan de refuerzo ya se estaba haciendo previamente

es decir actuaciones de la inspección de trabajo que se realizan como antes apuntaba con sistemática habitualidad y con carácter prioritario en el ámbito de las contrataciones temporales es por ello que presentamos enmienda al texto original instando al gobierno a continuar

que ya se están realizando a seguir intensificando las tareas de inspección

sentido siempre que usted que se inste a este gobierno a hacer algo que ya está haciendo su iniciativa evidentemente contará con el apoyo de nuestro grupo

de la inspección de trabajo es sin duda una herramienta en la lucha contra los contratos temporales fraudulentos

referencia a otras dos cuestiones esenciales en esta lucha por un lado el cambio normativo

usted es consciente que el cambio normativo es la primera línea de ataque en la lucha contra el fraude en los contratos temporales

sobre la inspección sin tener ordenadas las cosas aguas arriba en madrid de hecho su partido ha presentado estos días un nuevo modelo laboral simplificado en tres contratos indefinido temporal y formación si ustedes tienen posibilidad de implantar ese modelo esperamos que lo hagan que lo implanten alguna vez ya han tenido oportunidad y no lo han hecho

que no les pase como al partido popular que también realizó anuncio de simplificación en esta cuestión y sin embargo en la reforma laboral pasaron de cuatro a cinco los tipos de contrato a nuestro juicio la simplificación en principio es buena pero lo que realmente es importante es el contenido la definición de cada tipo

cuestiones como la duración máxima en el tiempo de contratación temporal son esenciales usted me dirá

de su iniciativa así por ejemplo lo ha hecho el señor maneiro no en la parte justificativa en este caso

el primero de sus párrafos de la parte dispositiva defendiendo su apuesta por el contrato único cuestión que no compartimos por encorsetado pero

o echamos en su día cuando analizamos su iniciativa de menos en su texto inicial la referencia a los creadores de empleo si bien desde las instituciones hay que crear las condiciones necesarias para que pueda desarrollarse el empleo

las que fundamentalmente lo crean y es por ello esencial

a incrementar las contrataciones indefinidas por la mayor estabilidad que dan tanto a las propias empresas como a los y a las trabajadoras y al conjunto de la sociedad

que después de las conversaciones previas se ha visto recogido en el texto final consideramos que mejora sustancialmente

ese texto inicial creo importante para terminar subrayar destacar

hecho en esta cuestión que ha terminado con un alto grado de consenso alrededor

bueno no era intención intervenir porque a partir del amplio acuerdo alcanzado pues pensaba que era ocioso añadir nada más no obstante el señor aiartza ha hecho varias apelaciones a mi persona y esto

a tener que bajar usted dice que el cambio de la normativa

hablamos en fraude de ley de la normativa vigente que hay que cambiar la normativa lo comparto plenamente sobretodo todo lo que tiene que ver con la reforma laboral de dos mil doce hay que cambiarlo pero hablamos del fraude en la contratación constante el derecho positivo el derecho vigente que en fin que ya es bastante restrictivo desde el punto de vista del derecho de los trabajadores

es evidente es palpable y además todos hemos coincidido en esa idea de que subyace en mucha de esa contratación temporal que ya es la mayoritaria en toda la nueva contratación que es abusiva por muchas razones y he dicho que no iba a entrar en la casuística porque eso efectivamente usted me ha pedido o me ha requerido de que hubiera

digamos el contenido de la iniciativa pero bueno en fin entendía que el objeto el propósito general de la misma estaba claro

eso es lo que tengo que decirle respecto de que el gobierno viene trabajando yo siempre digo lo mismo

es que acuerdos anteriores en materia de reforzamiento

incluso la promesa del consejero anterior

creo que eran dos más por cada territorio hasta un total de seis

cubrir por lo tanto lo que quiero decir señor aiartza es que más allá de los discursos y más allá

que esto se traduzca en una acción concreta y que se materialice yo no sé cuánto tiempo puede tardar el gobierno y sus servicios jurídicos en sacar una oferta pública de empleo para cubrir esas vacantes

pero entendemos que entretanto están ocurriendo estas cosas

respecto de que hay una coincidencia temporal entre esta iniciativa y lo que ayer planteaba el secretario general del partido socialista pues debo decirle que toda esa doctrina me la tengo que embeber a partir de ahora porque

sus trabajos al día estas iniciativas se registran con cierto tiempo de antelación que hayan coincidido en esta fecha

más que con el hecho de que pedro sánchez ayer tuviera una intervención en el congreso de los diputados nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna